que este no debate porque no es un debate

la otra parte fuera rusia no tendríamos este debate no estaríamos en este debate como no lo hemos estado cuando ha sido con otros estados tratados de libre y comercio por qué tenemos este debate porque en la otra parte está y entonces a algunos se le ponen ya los pelos como escarpias y entonces ya vienen todos los males del mundo mundial si fuera

el señor matute no nos hubiera traído este tema aquí que ya lo debatimos hace lo debatimos en el anterior período de sesiones

seguiremos sin acuerdo porque estamos debatiendo el no acuerdo que es que también de vez en cuando hay que recordar aquí cómo son las cosas y yo ya le dije

no creo ya sé que usted en los españoles no confía nada pero no creo que ni los alemanes ni los británicos ni los franceses o sea el resto

se dejen engañar por los americanos y hagamos el primo todos los europeos claro y

que ni el partido popular europeo ni el partido socialista europeo estaban de acuerdo con la propuesta

en cuanto al tribunal y como usted sabe cuando hay más de doscientos enmiendas se puede retirar para ver si se ponen de acuerdo ahora fíjese usted

que regula tantas cosas para establecer posibilidades de comercio entre europa y estados unidos

la gran discusión sea el tribunal que tiene que juzgar si alguien incumple esa fue la discusión ayer en europa no lo que usted nos ha traído aquí porque nos ha vuelto a repetir los mismos recursos de hace seis meses la educación la sanidad

las relaciones laborales se van a ver afectadas mire le voy a poner un ejemplo usted cree que la unión europea es más o menos que el tratado de libre comercio con estados unidos es más o es menos es más no

y las relaciones laborales de los estados miembros de la unión europea son todas las mismas o son distintas

a santo de qué se tiene que venir aquí a inventar peligros o cosas que ponen en riesgo no busque argumentos

y que no hace falta para nada esgrimirlos y menos le repito cuando no hay texto

claro hoy no es que no recuerdo yo que ningún otro tratado se haya discutido perdón un borrador

que se haya discutido en el parlamento europeo y que se presenten enmiendas

que todos los grupos han podido presentar enmiendas al borrador para hacer recomendaciones a la comisión negociadora

no sé en que país vive o en que país cree que vive cómo se aprobaría

concluidas las negociaciones supuestamente hay un acuerdo de la comisión negociadora

de la unión que debe aprobarlo por el cincuenta y cinco por ciento de los estados que deben representar al sesenta y cinco por ciento de la población

que lo tiene que aprobar y después tiene que ser ratificado por los estados miembros sí

fíjese que si hubiera acuerdo hoy para cuándo estaríamos hablando que entre en vigor si es que

ese acuerdo usted dice no esto solo beneficia a las multinacionales se lo han dicho ya pero si las multinacionales usted no sé que multinacional cree que no está en españa

igual hay alguna no sé pero vamos yo creo que están todas y en europa es que no se me ocurre cuál no está operando

y además operando en función de las legislaciones que en cada sitio les beneficia mejor

y haciendo trasvases de fondos de unos sitios a otros para ver si así

que la regulara verdad pues a lo mejor podría limitar esas pequeñeces quiénes serían los beneficiados mire se lo han dicho también

y los ciudadanos y por qué las pequeñas empresas porque podrían vender productos más baratos porque se retiran aranceles

sí y qué quiere que le diga yo no tendría ningún problema en aceptar también y me parece bien que se firme uno con rusia y con los países del este

y con los de todo el mundo porque eso es bueno para todo el mundo no sé usted a qué es a lo que le tiene miedo yo pensaba cuando era más joven que la izquierda se caracterizaba por una cosa que era en internacionalismo

a todos los efectos y a todos los niveles y lo que está defendiendo es siempre poder decidir en el ámbito más pequeño todo bueno pues así

el esquema de la derecha más rancia y caciquil de cada pueblo se lo están aplicando ustedes perfectamente y por lo visto han dejado de ser internacionalistas o a lo mejor es que eso ya solo se oponen si es estados unidos

yo creo que su léxico le pone en evidencia hablar de países del este en el dos mil quince podría ser cualquiera del mundo en lugar de donde se mire supongo que usted habla de los países del otro lado le informo

que luego fue diputado de upyd y en una serie hacía de señor que se había quedado en coma durante mucho tiempo y luego vuelve a la vida le informo y si no vea good bye lenin que el muro ya cayó cayó en mil novecientos noventa

tampoco hace falta volverse estajanovista pero un poquito más a mí me parecía mal un acuerdo comercial con este si se firmará con rusia porque putin no es santo de mi devoción tampoco lo es china para que

que lo que yo haría para con sus desmanes por tanto no se trata de una lógica de confrontación de la de mil novecientos noventa para atrás porque yo sí sigo defendiendo el internacionalismo pero incluso hasta el internacionalismo proletario señor damborenea probablemente por eso

y como poco más ha dicho que eso poco más le puedo decir si acaso si acaso decirle

no es hoy el mayor motivo de mis preocupaciones y supongo que ni de los de la mayoría de esta cámara

que a lo que vaya a salir de esta votación pero volviendo al tema usted y también el partido socialista

en el texto que han firmado nos señalan una serie de cuestiones que consideran que van a conseguir que se excluyan del tratado o de la negociación final si yo se lo he dicho antes con claridad

que es un tratado de última generación al igual que lo va a ser este el propio nafta que es un tratado muy equivalente a este ya incorpora la cláusula del trinquete

que lo que se saca fuera de la negociación en el transcurso de la misma pueda ser incorporado con posterioridad sin necesidad de ser sometido nuevamente a ningún tipo de control público ni político

que les haya movido a hacerlo no es sino papel mojado porque la esencia del propio tratado en la forma en la que se construye como tratado de última generación que incorpora la cláusula trinquete

porque después las transnacionales y es así puedan incorporar a posteriori todo lo que quieran esa es la verdadera trampa por eso

lo que pongo en cuestión es que no se den cuenta de lo que les estoy contando y sinceramente no me lo creo no me lo creo y como no me lo creo lo dejó ahí porque si no creo

lo que me queda por concluir es todavía peor y seguramente estropearía aun más nuestras ya de por sí parece que devaluadas relaciones

para nosotros este es un ejemplo muy claro del esquema de confrontación entre dos modelos pero eso

y evidentemente he dicho que en esa consulta ustedes defenderán las bondades de ese acuerdo final y nosotros

supone para el conjunto de la población no le he planteado más que un escenario donde aparentemente y a priori partamos en situación de igualdad para además depositar toda la decisión en la ciudadanía

utilice el dato de las asistencias a las manifestaciones como un elemento que dice que no va a utilizar

pues qué sé yo de la asistencia a no sé que mítines suyo y luego la realidad me diría lo contrario por ejemplo en lazkao

ustedes votaron en contra del referéndum y lo votaron el zazpide mayo de dos mil catorce con el pp con el psoe

esa es la votación que promovió izquierda plural y a la que ustedes en los dos primeros puntos votaron en contra

socialista y con las cuestiones que ha dicho yo no vengo a vender aquí nada yo vengo a trasladar una posición de confrontación del conjunto

defiendan y expliquen como quieran lo que tengan que explicar pero no se trata de vender nada les he planteado que se puede hacer la consulta yo no les he dicho cuándo por tanto no está fuera de lugar aunque no haya texto ahora se hará cuando haya texto bien pactemos eso

que haya un compromiso en esta cámara para que se haga cuando se conozca el texto ustedes a eso

con todo el respeto que usted me hable de coherencias cuando probablemente ha hecho una digestión muy forzosa de lo que supuso

provoca cierta hilaridad cierta hilaridad no demasiada pero cierta hilaridad y hombre que me aluda a los resultados para la reflexión que tengamos que hacer

que los suyos sean para lanzarse a la euforia más desbordante eskerrik asko matute jauna

y le he hecho una reflexión sobre esa consulta no estamos analizando ni resultados electorales ni nada ustedes ustedes

y ha tenido y no lo han negado ustedes en sus análisis electorales

votos en gipuzkoa eso es lo que hay de todas formas en cuanto

estamos tratando vamos a ver efectivamente nosotros vamos a tratar de condicionar todo lo que se pueda el acuerdo

y demócratas en el parlamento europeo y lo vamos a seguir haciendo mientras tengamos posibilidad de hacerlo y en concreto en concreto

a contestarle pero usted ha dicho que no se garantiza o sea que no había para nada transparencia

en las discusiones en la comisión de comercio internacional se han aprobado

posiciones concretas para que tome en cuenta la propia comisión negociadora y

que habla de transparencia participación de la sociedad civil y difusión pública y política lo que se aprobó el veintiocho de mayo es aumentar la transparencia de las negociaciones poniendo propuestas de negociación a disposición del público en general

el acceso de los diputados del parlamento europeo a todos los documentos de negociación también los textos consolidados

y puedo seguir leyendo hasta siete puntos al respecto de garantizar la transparencia

y sobre el tema de los servicios sociales también está el apartado

y dice garantizar el más elevado nivel de protección de la legislación en los ámbitos de la salud y la seguridad así como de los consumidores laboral medioambiental y de bienestar social y con respecto

a la normativa y a los acuerdos de la oit los acuerdos por enmienda del grupo socialista y que

en esa comisión de comercio internacional se dice garantizar que el capítulo de desarrollo sostenible es vinculante tiene fuerza ejecutoria y tiene como objetivo la ratificación aplicación y cumplimiento plenos y efectivos de los ocho convenios fundamentales de la organización

el programa de trabajo decente de la oit y los acuerdos internacionales fundamentales en materia de medio ambiente

los niveles de protección de los estándares laborales y medioambientales esto es lo que se ha aprobado el día veintiocho esto es lo que está sobre la mesa

y lo que posiblemente se vuelva a votar por el parlamento europeo

para guiar a la comisión en su negociación este es el esfuerzo que se está haciendo y

porque el acuerdo puede no ser bueno y el acuerdo puede no ser apoyado por los grupos que hemos apoyado estas directrices porque hemos apoyado fijar una posición

pero no hemos dicho que estamos de acuerdo con él que votamos a favor de cualquier acuerdo estamos a favor de la negociación y una vez concluida la negociación se tomará postura a la vista

en cuanto a la enmienda transaccional efectivamente no apoyamos la consulta pero si ustedes se fijan en el último punto

desde la sociedad civil y las instituciones vascas se haga una campaña de información a la población sobre estos asuntos porque como he dicho en mi primera intervención

de la ciudadanía lo primero que tiene que haber es toda la información posible al respecto y eso es lo que nosotros proponemos muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna

lo único que estaba comentando es que ekologistak martxan en su página web da noticia de las manifestaciones que fueron convocadas ese día diecinueve de abril contra el ttip y dice que fueron un éxito simplemente he leído las cifras que daban ellos

sorprendente en que haga usted este tipo de alusiones es un pequeño acto electoral

en el cual alguna silla está ocupada y además se ven las sillas del bar de atrás pero bueno si este es el nivel de un debate parlamentario pues asumámoslo en cuanto

el error el error y la votación usted alude a una votación del año dos mil catorce de una iniciativa de izquierda plural yo le he leído el párrafo literal

a iniciativa de amaiur en ese sentido a lo mejor la enmienda ya está hecha

efectivamente primero estamos hablando de un tema que se está negociando lo que estamos apelando todos es a que las instancias concernidas por esa negociación de manera directa

que últimamente parece que se está dibujando pero durante mucho tiempo ha sido opacidad absoluta la que se ha planteado en esas negociaciones en el primer punto de nuestra enmienda de transacción solicitamos a la comisión europea que

usted mismo ha dicho que no se da tanto es así que los señores europarlamentarios tienen que meterse en un pequeño cuartito con un papel

bajo la atenta mirada de un funcionario de confianza de se supone el consejo de europa de turno a la comisión europea de turno y en base entonces a qué pretende usted a qué información pretende usted que se convoque una consulta a los apuntes tomados a lápiz por determinados europarlamentarios lo que nosotros instamos

firmado y que supongo que se aprobará en buena lógica es precisamente al gobierno de madrid a que informe al gobierno vasco

de que disponga al respeto de este tema en cumplimiento

en la elaboración de los tratados y convenios así como de los proyectos de legislación aduanera en cuanto afecten a materias de especifico interés para el país vasco

que el contenido del ttip afecta de manera directa a competencias del país vasco y por tanto entendemos que en cumplimiento de ese artículo veinte punto cinco

del señor rajoy o el que venga después tendrían que informar de la manera debida al gobierno vasco hasta la fecha desde luego no lo han hecho lo que no sé es si por pecado de opacidad propio o a su vez sufre esa opacidad que usted afirma que existe con tanta contundencia y que probablemente desde luego hasta hace muy poco así era

no sabía yo que los países del este de europa ya no están al este de europa sino que están en otro sitio hasta donde yo sé no se ha movido ninguno

y el vecino de al lado lo ha invadido entonces si usted se estaba refiriendo a políticamente

verdad porque eso si que ha ocurrido en el caso de ucrania la negociación con la unión europea causa suficiente

me dice usted ya las paranoias para inventarse que es que las transnacionales después de firmar van a poder meter cosas en el texto oiga

el texto si es que al final hay texto no puede venir diciendo que si una transnacional

va a alguien a modificar los textos aprobados en la unión europea en el parlamento europeo y en los estados miembros y yo solo le voy a recordar una cosa

en el año noventa estamos en el dos mil quince

a iniciativa de la unión europea nunca se avanzó nada así que supongo que las transnacionales americanas no estaban muy interesadas en el tema

que hay un presidente que se llama obama porque con los anteriores se avanzó cero

y a lo mejor porque tienen ese presidente a la vez está negociando

y a lo mejor cuando deje de estar no se preocupe usted que a lo mejor seguimos sin ningún tratado

con lo cual usted aplaudirá mucho se lo pasará muy bien

paso a defender una iniciativa que fue registrada el pasado día quince de diciembre no se ha debatido hasta hoy porque estaban pendientes las comparecencias de una serie de personas cuyos relatos podían ser interesantes para aportar luz

comparecido en la comisión correspondiente pero en todo caso tenemos ya la información suficiente conocemos los hechos como para no solamente defender la iniciativa original sino para defender una transaccional que hemos firmado con el grupo popular una transaccional que es más completa
isiltasuna mesedez que es más completa que la iniciativa

recoge algunos planteamientos recogidos en la enmienda de totalidad o en la proposición no de ley que el grupo socialista registró y que quizás no tan sorprendentemente hoy por la mañana ha decidido retirar nosotros en esta enmienda transaccional firmada

proponemos básicamente dos cosas que el parlamento vasco requiera a los representantes del gobierno vasco en el consejo de administración de metro bilbao que promuevan el cese y la destitución inmediata

gerente el señor eneko arruebarrena y por otro lado pedimos que este parlamento repruebe la actitud en nuestra opinión

de la consejera de medio ambiente y política territorial por su negativa durante todos estos meses a la vista de todos a rendir cuentas sobre la actividad de control

esto que aquí se propone esto que he firmado con el grupo popular es algo que durante los últimos meses hemos venido defendiendo

salvo el grupo nacionalistas vascos finalmente se ha firmado una transaccional entre el grupo socialista y el grupo nacionalistas vascos cuyo objetivo fundamental es taparse sus vergüenzas como luego explicaré yo no voy a entrar a explicar de manera pormenorizada

escándalo pinosolo conocemos todos perfectamente qué es lo que ha ocurrido ahí pero quiero al menos esquemáticamente sucintamente

todo lo que ha ocurrido en este escándalo durante los últimos años y de qué estamos hablando cuando hablamos de pinosolo estamos hablando de

del sector público estamos hablando de una pésima gestión desarrollada por el ayuntamiento de leioa estamos hablando de derroche de dinero público estamos hablando de clientelismo político

pelotazo urbanístico hablamos de viajes gratuitos para cargos públicos pagados por empresas adjudicatarias estamos hablando de amenazas

influencias hablamos también de puertas giratorias o recolocación de cargos públicos en determinadas empresas públicas en este caso concreto la recolocación

como gerente de metro bilbao estamos hablando de discrecionalidad y arbitrariedad

del complejo deportivo pinosolo según la propia autoridad

en obras públicas hablamos de manejo de información privilegiada y de perjuicios para terceros hablamos en definitiva de indicios claros

muchas de estas cuestiones han sido recogidas fueron recogidas en el dictamen y en las conclusiones del dictamen de la comisión de investigación

no contó con la colaboración y la participación ni del alcalde del partido nacionalista vasco ni del concejal del mismo partido el señor jon loizaga se negaron a participar se negaron a colaborar en esa comisión de investigación a pesar a pesar de esos obstáculos puestos por el partido nacionalista vasco para saber exactamente qué era lo que allí había ocurrido se pudo saber qué era lo que había ocurrido y tenemos

muy contundente en relación a este escándalo escándalo de pinosolo y que habla de irregularidades habla de despilfarro y de mala gestión y que señala

responsabilidades políticas por lo tanto digamos que estos dos puntos que nosotros defendemos en esta transaccional son defendidos de manera paralela pero de manera separada una cosa son las irregularidades producidas en el caso pinosolo una cosa el despilfarro de dinero público que se ha producido en relación a ese escándalo una cosa es en fin las responsabilidades políticas señaladas

la actitud absolutamente inaceptable de la consejera de medio ambiente y política territorial durante todos estos meses a la consejera de medio ambiente y política territorial en este parlamento se le ha preguntado en varias ocasiones por este asunto por parte de diferentes grupos y permanentemente una y otra vez la señora consejera

a responder a los grupos parlamentarios se ha negado a hablar de la cuestión sobre

haciendo gala de una prepotencia absolutamente inaceptable y de una falta de respeto que nosotros por lo menos queremos condenar y rechazar contundentemente en este parlamento preguntas orales interpelaciones y su propia comparecencia una absoluta la actitud de la consejera de medio ambiente y política territorial esta es una decisión que tomó libremente ella

podía haber comparecido en esa comisión para explicar su posición y la posición del gobierno en relación al mantenimiento de eneko arruebarrena como gerente del metro bilbao no lo hizo no quiso hacerlo

y faltó al respeto absoluto de la cámara por eso enmienda de transacción firmada con el grupo popular recoge esos dos puntos diferenciados que hacen referencia o surgen de un mismo caso pero que responden a situaciones distintas por lo tanto pedimos

inmediata al señor eneko arruebarrena y también pedimos que vista su actitud este parlamento repruebe a la consejera por su inaceptable comportamiento durante todos estos meses yo mismo era partidario de pedir directamente la destitución de la señora consejera

nadie le obligó a comportarse de esa determinada manera lo hizo libremente lo hizo porque quiso lo hizo sin ningún tipo de explicación más que

del gobierno vasco finalmente hemos asumido el planteamiento inicialmente planteado con acierto por el grupo socialista que llamaba a la reprobación de la propia consejera por eso hemos firmado esa transaccional con el grupo popular por un lado destitución inmediata

reprobación de la consejera por su actitud el grupo socialista

ha pactado con el grupo nacionalistas vascos ellos sabrán el contenido de sus pactos secretos tendrán ocasión de explicarlos también en relación a esto que ustedes han firmado tendrán que explicarlo a sus militantes tendrán que explicarlo al conjunto de los parlamentarios que forman su grupo parlamentario tendrán que explicarlo a la sociedad pero tengo que decir que a mí me parece ciertamente un acuerdo absolutamente vergonzoso el grupo socialista ha sido

durante todos estos meses en relación al escándalo pinosolo el grupo socialista preguntó a la consejera sobre la cuestión el grupo socialista consideró

el grupo socialista redactó una enmienda de totalidad pidiendo la reprobación de esta consejera y resulta que hoy por la mañana nos presentan una transaccional

para salvar a esta consejera ustedes sabrán por qué es evidente que es un pacto otra vez entre el grupo nacionalistas vascos y el grupo socialista para taparse sus propias vergüenzas para defender sus propios intereses partidarios pero en fin esto cada cual lo valorará como considere nosotros hemos sido coherentes a lo largo de todos estos meses el grupo popular ahí está su enmienda y aquí esta la firma transaccional agradezco al grupo popular su voluntad para firmar esa transaccional el grupo eh bildu también ha sido contundente durante

a todo este asunto supongo que votará también a favor de esta transaccional no vamos a conseguir seguramente que salga este acuerdo porque el grupo socialista otra vez

decide pactar a última hora con el grupo nacionalistas vascos para

salvar al gobierno y dicho esto y para terminar en relación a esta cuestión tengo que decir también que me parece absolutamente inaceptable

que se hayan impedido las comparecencias de diferentes personas

tengo que decir que nosotros pedimos la comparecencia de tres personas que tenían mucho que decir sobre esta cuestión allá por el mes de diciembre del año dos mil catorce y hasta esta misma semana

en primer lugar la comparecencia de estas personas y después la mesa de la comisión correspondiente impidió que esas comparecencias

de respeto no ya al parlamento sino al conjunto de los ciudadanos impedir que una serie de personas que tienen mucho que decir en relación a esta cuestión finalmente no compadezcan para que los ciudadanos no puedan conocer

esto también por lo tanto es lamentable en fin todo esto explica por lo tanto la firma de esta transaccional dos puntos claros

han sido defendidos por todos los grupos de la cámara salvo el partido nacionalista vasco hasta hoy mismo por la mañana el grupo socialista decide finalmente ayudar al partido nacionalista vasco
a tapar sus propias vergüenzas ciertamente lamentable eskerrik asko maneiro jauna

gracias señora presidenta buenos días casi buenas tardes ya

es cierto que íbamos a debatir al final solamente una pero íbamos a debatir

iniciativas relativas a lo que se conoce y se conoce bien como el caso pinosolo es verdad que nuestro grupo

aparece incorporada como enmienda y en las dos iniciativas que iban a ser debatidas pero finalmente en la enmienda de transacción que hemos firmado con el grupo upyd se debaten los distintos prismas de este asunto que también habían sido planteados por este grupo tanto a través de esa iniciativa como digo que no puedo ser debatida como las preguntas que

a la consejera yo sí quiero referirme a lo ocurrido en leioa porque eso explica el por qué de las peticiones que se contienen en esa enmienda a finales del año pasado concluía

para esclarecer y en su caso determinar la existencia o no de responsabilidades políticas en torno a este asunto

en el que órgano que residía la representatividad de los vecinos de leioa y esas conclusiones no dejaban lugar a dudas más bien todo lo contrario lo que hacían era poner

una multitud de irregularidades una cantidad enorme de decisiones en el mejor de los casos equivocadas y una gestión y económica que no se puede calificar más que como absolutamente nefasta a ello hay que sumarle una actitud que se ha demostrado

de absoluta falta de respeto institucional efectivamente la gestión económica en torno a este asunto ha sido en leioa manifiestamente mejorable estamos sin duda ante el polideportivo más caro de la historia de euskadi un polideportivo fantasma

de euros sin perjuicio de las indemnizaciones que después se puedan derivar además de eso teníamos otro proyecto el de las piscinas torresolo que había hubo un incremento de un cincuenta y cuatro por ciento del precio inicial es decir

que alcanza casi los cuatro millónes de euros con estos antecedentes lo que nos preguntábamos la pregunta

ninguna duda hacerse es si el señor arruebarrena ofrecía garantías para gestionar adecuadamente una entidad como metro bilbao que maneja un presupuesto importante y en segundo lugar también hay que reflexionar como decía sobre la actitud del señor arruebarrena y sobre si le es de aplicación o no en su caso el código ético como he dicho antes el exalcalde de leioa ha demostrado un nulo respeto institucional

se ha negado a comparecer hasta en dos ocasiones en la ponencia de investigación creada en el ayuntamiento demostrando con ello una nula voluntad política de arrojar un mínimo de luz que ayudara a esclarecer lo ocurrido una actitud incomprensible e irrespetuosa fundamentalmente con los vecinos de leioa que fueron quienes

se debía les debía las explicaciones y esta actitud ha persistido después

no ha sabido dar la cara y solamente vino a esta cámara porque fue citado por lo tanto es merecedor de una absoluta arrogancia y cobardía

y actitud que como digo reiteró aquí que solo vino por obligación como ha dicho el señor maneiro yo quiero recordar en este proceso ha habido cuestiones muy serias y muy graves

políticos que continuaron en su cargo con la quiescencia del señor arruebarrena

dimisiones de funcionarios por ser literalmente apartados de cualquier toma de decisiones publicaciones

con un año de antelación al inicio del proceso de licitación de detalles muy concretos del proyecto que después resultó ganador adjudicación a una empresa concreta a pesar de que el proyecto ganador presentaba graves deficiencias y diferencias

selección ad hoc de las empresas evaluadoras de los proyectos filtración del informe elaborado por una de las empresas que inicialmente había sido seleccionada para evaluar y que tras que conocerse la existencia del famoso plan fue apartada pero eso sí

se les filtraron a la tercera empresa que le sustituyó contaminando de esta forma totalmente el proceso de selección de las ofertas presentadas varios son los protagonistas

máximo responsable político como dije cuando se sustanció la pregunta oral

fomentar la actuación eficiente en la gestión política así como para preservar y reforzar la confianza ciudadana estas normas consisten en la excelencia en la eficiencia en la imparcialidad en la transparencia en la objetividad

son valores que son consustanciales o por lo menos deben serlos a la gestión de cualquier responsable público nosotros se lo dije en su momento a la consejera

todos estos planteamientos planteamientos que en teoría y en su totalidad estaban contenidos en el código ético aprobado por el gobierno pero desde luego

es totalmente contrario a estos principios

del código ético y lo mismo cabe decir de la actitud mantenida por la señora consejera que en las respuestas que nos ha dado tanto a la pregunta como después

ético no es más que papel mojado para ella una simple declaración de detenciones que no tiene ningún valor un mero trámite desde luego

al que ni el señor arruebarrena ni la propia consejera se quieran someter se le pidió explicaciones explicaciones

con esos precedentes con esa gestión económica nefasta con esa falta de respeto institucional

estaba en condiciones de mantener en su puesto y se limitó a hablarnos del número de viajeros del metro y de la puntualidad del metro es una falta absoluta de respeto a esta cámara una falta absoluta de respeto exige la verdad es que esta consejera

lo que no se ha aplica así mismo y en vez de reconocer que verdaderamente la actitud del señor arruebarrena no le hace merecedor en absoluto de mantenerse

ninguna de las características de un código ético al que se supone que debiera someterse no le hace merecedor de continuar en el puesto en el que está lejos de reconocer eso lo que hacen es una huida hacia adelante y contestan con evasivas pues bien más allá es verdad que el caso está judicializado y más allá de las responsabilidades que en su caso los tribunales puedan o no puedan determinar lo que está claro y lo queremos volver a reiterar aquí

en su gestión pública desde luego ha demostrado que lo ha hecho de forma absolutamente inadecuada

irresponsable causando un grave perjuicio económico y desde luego su actitud en ese momento durante todo ese proceso durante toda la comisión de investigación y después ha sido absolutamente contrario a la ética no conoce lo que es la excelencia

lo que es la eficacia lo que es el respeto institucional ha habido fundadas sospechas de posibles corruptelas se ha incumplido

nosotros hemos firmado esta transacción que era formaba parte de nuestra enmienda de nuestra iniciativa original que es pedir que se haga todo lo posible para cesar de su cargo al señor arruebarrena pero también

una iniciativa que ahora parece que ya se ha retirado y es reprobar la actitud de la señora consejera porque también ha demostrado una falta absoluta de respeto

gracias presidenta bien los socialistas sobre este asunto hemos mantenido siempre

el criterio de solicitar la aplicación estricta del código ético por parte del gobierno vasco respecto a la función que ahora ocupa el señor arruebarrena anteriormente

para conseguir titulares y lucirse sino para ser aplicado fue en su momento una iniciativa unilateral del gobierno y vincula a los altos cargos nombrados por él y nos parece bien fíjense si nos tiene que parecer bien que lo que el actual gobierno vendió como innovador ya lo hacía el anterior gobierno

para exhibirlo en una vitrina sino para ser cumplido de verdad para que los ciudadanos puedan percibir que las actuaciones públicas están presididas por la honestidad por la buena gestión por la ejemplaridad y por la transparencia y resulta a todas luces evidente que esos principios quedan bajo sospecha desde el momento en el que uno de los cargos públicos designados por este gobierno

ha demostrado a nuestro entender carencias notables a la hora de gestionar los recursos públicos es verdad que este episodio se refiere a su gestión como alcalde de leioa

parece que es un relevante puesto público y ahora ocupa otro relevante puesto público donde también debe gestionar dinero público y esa es la cuestión que nos trae aquí no si se abre o no apertura de juicio oral no se trata aquí de cuestionar la responsabilidad civil o penal del señor eneko arruebarrena sino de

acreditar como así pensamos nosotros que a nuestro entender ha quedado cuestionada

como gestor público y nos llama la atención muchísimo la atención la reticencia de este gobierno a actuar en esta materia

al conocerse una denuncia que cuestionaba una actuación privada como administrador concursal antes de incorporarse al ejecutivo fue no la oposición el propio lehendakari quien elevó el caso a la comisión ética y a los socialistas nos pareció bien

que quien debía ocupar un puesto de esa responsabilidad lo hiciera despejando de antemano cualquier sospecha el problema es que cuando existe en este caso concreto un trabajo de investigación municipal ampliamente compartido en el ayuntamiento de leioa

en contratos y en manejos poco claros y en todo caso poco eficientes el gobierno de eso no quiere hablar a pesar de que quien ahora dirige metro bilbao fue en aquel momento el máximo responsable del ayuntamiento de leioa

al que todos los demás consideramos que no es persona apropiada para dirigir el metro y los cuantiosos recursos asignados a esta infraestructura y queda claro

en este caso sí porque me viene bien y en este caso no porque no me interesa de ahí que sea tan importante disponer de una ley de transparencia que imponga de verdad obligaciones claras y no dependa como en este caso de compromisos de libre adhesión una ley por cierto que sigue

por la torpeza de este gobierno quiero recordarles que el principal argumento que nosotros es que vinimos para expresar nuestro rechazo a la normativa de transparencia propuesta por el gobierno fue

su carácter timorato en cuanto a la exigencia a las distintas administraciones y que además carecía de un régimen sancionador en caso de incumplimientos

esa ley corta que trajo el gobierno estaba en marzo en fase de tramitación y su formulación mostraba la poca convicción que tenía el gobierno en una apuesta de verdad por la transparencia radical y los hechos lo demostraron entonces porque en esas mismas fechas se tendió una cortina protectora hacia un alto cargo el señor arruebarrena cuyas deficiencias de gestión de lo público habían quedado expuestas en un puesto anterior y se produjo entonces la bochornosa lamentable

en la comparecencia en este parlamento respecto al puesto de metro bilbao ocupado por el señor

para otro lado porque bochornoso lamentable e irrespetuoso es que se le cuestione a la consejera sobre las razones

a alguien que ha demostrado sus limitaciones gestoras y que ella responda esa pregunta ponderando la puntualidad del metro es una falta de respeto

si tenía intención de remitir este tema al código ético sí o no

en la puntualidad de los vagones del metro eso es una falta de respeto a esta cámara

o una disculpa por su parte porque cuando los parlamentarios pedimos aclaraciones se nos tienen que dar eso además de ser lo reglamentario y lo políticamente exigible también está recogido en el código ético aprobado por su gobierno vuélvaselo a leer con detalle y sobre todo apliquen con rigor

la transparencia y la honestidad en el ejercicio del cargo público aquello de que no solo tiene que serlo sino parecerlo el gobierno tiene ya escrito lo que tiene que hacer y por eso es de sentido común que como señala la enmienda de transacción que ha aceptado el partido nacionalista vasco someta

a la vista de las irregularidades detectadas en la construcción del polideportivo de pinosolo cuando él ocupaba la alcaldía de leioa

lo que nos hubiéramos ahorrado todos si desde el minuto uno ustedes hubieran puesto en marcha un procedimiento que fue establecido por ustedes cuando entraron a este gobierno

si se pretende ser coherente con los compromisos asumidos en el código ético lo que no entendemos es por qué no se hizo desde el primer momento antes de que los partidos de la oposición pusieran de relieve la incongruencia absoluta de situar en un cargo de gran responsabilidad a quien se había revelado como un mal menor cuanto menos como alcalde de leioa en cuanto a la consejera queremos que quede constancia de nuestro reproche más severo por una actitud

a esta cámara y a los parlamentarios y parlamentarias ante los que usted compareció

vamos a entender que esa actitud respondió a esa falta real de compromiso con la transparencia real que tiene el gobierno y que se reflejaba en el proyecto de ley de administración pública

a lo que la mayoría de este parlamento pensamos ya en noviembre

los socialistas mostramos nuestro rechazo a la actitud mantenida por el consejero portavoz con respecto a las polémicas ayudas al grupo noticias y la mayoría del parlamento entendimos que aquel reproche público era suficiente en este momento y en esta ocasión esperamos que la voluntad de acuerdo que dice tener el gobierno se demuestre con hechos reales tanto en la reformulación del proyecto de ley que se vio obligado a retirar

como atendiendo a la mayor diligencia por cierto a la solicitud que se le va a hacer desde esta cámara para que la comisión de ética pública dictamine si el alcalde de leioa cumple o no los requisitos que se ha autoimpuesto este gobierno para el desempeño de sus altos cargos concretamente en este caso
para estar al frente de metro bilbao eskerrik asko pastor jauna

y por otro lado además de la vertiente municipal está la vertiente en la que se cuestiona la capacidad de gestión y profesionalidad del director gerente de metro bilbao en la que el gobierno vasco como parte integrante del consejo de administración de metro bilbao tiene que valorar cuál es el trabajo que el señor arruebarrena ha desempeñado y está desempeñando

está fuera de toda duda y está avalada por la evolución de los resultados de la sociedad desde principios de dos mil trece que fue nombrado hasta la fecha algunos datos que ya facilitó la señora consejera se ha adelgazado la estructura directiva reduciéndose sustancialmente el coste se ha logrado la paz social acordando con la representación sindical un convenio colectivo para los años dos mil trece

los niveles de absentismo por enfermedad se han reducido hasta una cifra récord en metro bilbao los viajeros y viajeras que utilizan el metro para sus necesidades de movilidad valoran el servicio con una nota

se han recuperado servicios regulares y especiales que se habían reducido anteriormente el índice de cobertura de la sociedad alcanza el ochenta y cinco coma trece por ciento el mejor del año en un transporte público a nivel estatal la fiabilidad del servicio alcanza un noventa y nueve coma ochenta y seis y la puntualidad

repetidamente no les interesa no les interesa la gestión de metro bilbao la gestión del señor arruebarrena al frente de metro bilbao pero a la sociedad vasca sí

de metro bilbao y que demuestran que el señor arruebarrena está haciendo un buen trabajo al frente de metro bilbao

qué nos encontramos nos encontramos a unos grupos de la oposición que basan toda su argumentación en dos cuestiones en primer lugar en unas conclusiones de una ponencia de investigación celebrada en el ayuntamiento de leioa que como comprenderán cumple con todos los criterios contrarios a lo que debe ser la justicia nosotros entendemos que la justicia debe ser independiente e imparcial

parciales interesadas y partidistas ya que se trata de una ponencia política formada por los grupos políticos con intereses políticos que en varios casos convergen en su objetivo arremeter contra el partido nacionalista vasco y en segundo lugar algunos también lo basan en una resolución de la autoridad vasca de la competencia que sanciona a dos empresas pero no

ni a ningún organismo autónomo dependiente del ayuntamiento de cuyo máximo representante y responsable sería el alcalde y todo esto

para decir que los hechos están demostrados que los responsables están señalados

cargo público y porque no le pueden ejecutar incluso en la comisión se llegó a decir que la suerte estaba echada y solo faltó que el señor maneiro

emulando a algún emperador romano hiciese el gesto típico

y todo ello y hay que decirlo bien alto sobre una persona que ni siquiera está imputada señora llanos ni siquiera está imputada lo cual

entendemos que se olvidan de dos principios fundamentales de un estado de derecho democrático en primer lugar la separación de poderes

investigar juzgar y condenar y por otro lado la presunción de inocencia garantía consagrada en el artículo once de la declaración universal de los derechos humanos y en el artículo veinticuatro punto dos de la constitución española que constituye un derecho fundamental y uno de los pilares del ordenamiento jurídico en los estados democráticos tanto extraprocesalmente

y esto es a diferencia de un sistema inquisitivo en el cual bastaba que existiera una denuncia penal en contra de una persona y la referencia de su comisión por dos testigos

incluso se generaba un mandato de detención y esto es lo que ustedes pretenden un sistema inquisitivo respecto al planteamiento del señor maneiro no nos sorprende

mayor rigor y una mayor responsabilidad y la mayor parte de las veces pues ya hemos visto que actúa de oído buscando el titular por eso permítame un símil futbolístico señor maneiro

a usted le gusta jugar en el terreno embarrado y es más a usted mismo le gusta regar en exceso el terreno de juego para luego en su salsa intentar repartir leña a diestro y siniestro y jugar al patadón sin ningún pudor

decía también usted señor maneiro en la comisión de medioambiente y política territorial que esperaba que los ciudadanos actuasen en consecuencia y sí la ciudadanía y le ha demostrado también a ustedes a upyd que su estrategia de excesiva teatralización no es creíble en cambio sí nos sorprende sí nos sorprende la actitud del partido popular hombre que el partido popular se quiera erigir aquí en adalid de la ética política y en la limpieza de las administraciones que quiera darnos lecciones en esta materia pues bueno es

le voy a devolver las palabras que le dirigía en el pleno de contro a la señora consejera consejos vendo que para mí no tengo y abundando más voy a utilizar con el permiso de la señora presidenta una expresión que viene al hilo y que fue pronunciada por un

por supuestos temas de los que estamos hablando y que no por popular deja de ser soez pero creo que viene hilo su compañero trillo decía manda huevos pues sí manda huevos señora llanos bárcenas fabra blesa matas rato tranquila tranquila que no voy a enumerar todos

para mencionar a todas las personas del partido popular que están condenadas

provisionales judiciales sin entrar en otras cuestiones éticas la credibilidad en su partido de esta materia es cero

dos semanas nuestro grupo parlamentario nuestro partido tiene claro que hay que poner todos los medios posibles para acabar con la corrupción política y que hay que adoptar medidas contundentes contra los corruptos pero también

y establecer todas las garantías procesales necesarias para evitar adoptar medidas injustas ilegales irreparables y desproporcionadas contra una persona inocente nuestra enmienda de totalidad iba en la misma línea de lo planteado y aprobado por nuestro partido el partido popular sí señora llanos esto aprobó también su partido popular en juntas generales de bizkaia y el partido socialista en las juntas generales de bizkaia como decía hace unos meses a instancia precisamente del grupo socialista

apartar a los cargos públicos a los cuales se les incoe auto de apertura y juicio oral por delitos ligados con la corrupción y todo ello en aras a buscar un equilibrio entre la presunción de inocencia y el reforzamiento de la transparencia y la lucha contra la corrupción y en esta línea refrendamos lo manifestado en el escrito

toda actividad ilícita debe ser demostrada por lo menos a nivel de indicio de lo contrario se podría estar atentando contra el principio de presunción de inocencia y dado que el sistema penal español actualmente

a cualquier persona que esté denunciada como imputado a fin de garantizarles su derecho a una defensa justa entendemos más apropiado que en la medida de cesarle del cargo se tome en el momento en que se le incoe

esto decía y nosotros ratificamos plenamente en ese momento

imparcial e independiente entiende que hay indicios racionales de criminalidad kasu honetan

hemos llegado a una enmienda transaccional con el grupo socialista al que agradecemos su predisposición a llegar al acuerdo en el sentido de seguir manteniendo una aplicación estricta de los estándares

e instar al gobierno a trasladar a la comisión de ética pública la situación de la actual director gerente de la sociedad pública metro bilbao en relación

y todo ello a pesar de no estar afectado directamente por el código ético

afectados no obstante con esta transaccional nosotros nos sometemos al dictamen de dicha comisión besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

arduradun politikoak pinosolo no fue un caso aislado pinosolo muestra la manera en la que algunos entienden la política

viajes con dinero público presiones y amenazas a trabajadores ante las denuncias son algunos de los actos que ocurrieron en el ayuntamiento de leioa bajo el mandato de

el pnv decidió elevar a arruebarrena a director de metro bilbao

se hiciesen públicos está claro que arruebarrena ha conseguido blindarse como responsable público

y siempre con el amparo del ayuntamiento de bilbao y la diputación foral de bizkaia todas estas instituciones gobernadas por el partido nacionalista vasco

se tapan responsabilidades entre ustedes y se evita así dar explicaciones hoy parece que lo que era una postura clara por parte del grupo socialista ha decaído

con el pnv un texto vacío sin contenido y que cubre al pnv y sus vergüenzas de hecho por ello se lo han agradecido

han pesado más que la exigencia de aclaraciones y depuración de responsabilidades en un caso evidente de corrupción amiguismo y clientelismo político

hoy no es un día alegre en esta cámara hoy los políticos vuelven a taparse entre ellos para que no se conozca la verdad hoy una mayoría política negará depurar responsabilidades hoy la ciudadanía estará más alejada de lo que estaba ayer de la política y confiará aún menos en los representantes políticos

y es la que firman partido popular y upyd y tendremos que votarla con la nariz tapada

punto que ha desaparecido de su transacción pero siendo consecuentes con el voto positivo que íbamos a dar a las dos iniciativas que se traían hoy aquí el de votar a favor

es necesaria recuerdo por lo menos dos veces en los que la consejera a pregunta de este parlamentario en relación de su confianza sobre arruebarrena tras conocerse los datos de corrupción en pinosolo me ha respondido

sin embargo todavía desconozco cuál es la posición del gobierno en relación

está claro que la consejera no ha facilitado el control parlamentario está claro que su objetivo era tapar y desvirtuar el debate que se planteaba en el parlamento y está claro que la consejera no respeta a esta cámara no entendemos cuál es la razón por la que se ha retirado la iniciativa por parte del pse

por todo ello pedimos que nos respondan a una propuesta que les lanzo yo desde aquí y pido por favor que me respondan en su segunda intervención si para ustedes como así lo han manifestado por lo menos hasta ahora la actitud de la consejera no es aceptable para su nivel de responsabilidad

preparada la moción de censura de esta consejera

a presentarla si el resto de los grupos de la oposición apoya la propuesta no es cuestión de reprobaciones si existe un problema en el gobierno ayudemos

está dispuesto a hacerlo hoy vuelvo a repetir no es un día para alegrarnos con el resultado lo que se ha firmado y transado hoy el mensaje que lanzamos a la ciudadanía o por lo menos el que lanza el partido socialista euskadi y el partido nacionalista vasco

no pasa absolutamente nada y que los responsables de la corrupción son premiados y defendidos para que no tengan que pagar nunca por sus actos no es un día para que ustedes estén orgullosos aunque quizá el sábado en algún ayuntamiento
puedan hacerlo tras esto eskerrik asko

gracias presidenta enmienda del grupo socialista

a esta iniciativa presentada por upyd el parlamento vasco requiere a los representantes del gobierno vasco en el consejo de administración de metro bilbao

inmediata de su cargo del actual gerente director gerente eneko arruebarrena qué ha cambiado en las últimas horas para que ustedes hayan decidido esto que ustedes proponían a qué pacto secreto han llegado ustedes con el partido nacionalista vasco para proteger otra vez ya lo hicieron en el pasado al gobierno vasco

la verdad de lo que estamos hablando pueden ustedes explicar qué es lo que hay detrás de este acuerdo entre el partido nacionalista vasco y grupo socialista ya ha ocurrido por cierto en el pasado qué es lo que hay detrás de esto ustedes propusieron exactamente lo que está

de la transaccional iniciativa del grupo socialista registrada durante las últimas semanas sí retirada hace unas horas el parlamento vasco pide

de la consejera de medio ambiente y política territorial del gobierno vasco justo lo que está perfectamente recogido en esa transaccional y ustedes han retirado también esa iniciativa han decidido salvar otra vez al partido nacionalista vasco ha cambio

nosotros desconocemos y que si la conociéramos la denunciaríamos por lo tanto señor pastor en fin no tenga además el rostro de intentar mostrarse con el gobierno vasco ha pactado usted con ellos lo han vuelto a salvar dice que han firmado una transaccional que el partido nacionalista ha

a cambio de no se sabe exactamente qué otra vez porque hace algunos meses efectivamente ustedes decidieron a última hora votar en contra de la reprobación del señor

a última hora en el último minuto a cambio de no se sabe qué decidieron no reprobar al señor erkoreka decidieron no seguir adelante con aquella iniciativa decidieron salvarlo de una forma o de otra y hoy vuelven a hacer otra vez lo mismo

de la consejera y se han echado para atrás iban a pedir la destitución de arruebarrena y han decidido echarse para atrás a cambio de algún pacto secreto que nosotros desconocemos y evidentemente la transaccional nuestra es

justificada consideramos que esta persona que es gerente de metro bilbao no reúne las condiciones apropiadas para seguir en ese cargo porque tanto la comisión de investigación del ayuntamiento de leioa como los hechos que conocemos demuestran perfectamente sus responsabilidades políticas

estamos hablando de mala gestión estamos hablando de derroche de dinero público esto ha sido perfectamente demostrado no hace falta que la justicia lo diga hablamos de responsabilidades

un tribunal y hablamos de responsabilidades políticas y nosotros décimos que efectivamente esta persona no reúne las condiciones y tampoco reúne las condiciones para seguir siendo consejera

en la comisión insultó a los parlamentarios

ha insultado a los presentes y por cierto ha dejado en ridículo al grupo socialista señores del grupo socialista ustedes comparten

comparten su discurso comparten todo lo que han dicho porque hasta hoy mismo

justo lo contrario y me parece ciertamente asombroso que ustedes hayan firmado una transaccional avalando en fin el discurso del portavoz del grupo

de las responsabilidades políticas otra vez hablamos de la comisión ética qué pasa que este parlamento está secuestrado por la comisión ética qué pasa que los grupos parlamentarios no tienen opinión en relación a

qué pasa que nosotros no podemos debatir que los grupos parlamentarios no podemos tener una posición autónoma en relación a esta cuestión tenemos que pedir permiso a la comisión ética independientemente de lo que diga la comisión ética perfectamente este parlamento puede considerar que esta persona está incapacitada para seguir siendo

este parlamento tiene autonomía propia para considerar absolutamente lamentables las distintas intervenciones que ha tenido durante los últimos meses la consejera aquí presente que se negó permanentemente a responder a lo que se le preguntaba desde los diferentes grupos tenemos autonomía política otra vez la excusa de la comisión ética

hay razones perfectamente demostradas por lo tanto para afirmar y votar esta transaccional

yo conozco los hechos conozco el informe de la comisión de investigación conozco lo que

quien prefirió que determinadas personas que sabían mucho no comparecieran en este parlamento para que todos pudiéramos

es ciertamente lamentable que usted pretenda menospreciar el discurso de este parlamentario y sin embargo justifique el discurso y el comportamiento de la consejera ciertamente lamentable la actitud del partido nacionalista vasco esperada cierto
esperada eskerrik asko maneiro jauna pero que en este caso ha contado con la participación del grupo tendrán que explicarlo por qué pero ciertamente es lamentable eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea

bien señor pastor y señores socialistas yo no voy a interpelarles sobre su cambio de opinión ustedes son muy libres de hacerlo

de forma radical porque

de seguir manteniendo un aplicación estricta de los estándares de ejemplaridad y demás

luego dice insta al gobierno a trasladar a la comisión de ética pública la situación actual a trasladar ni tan siquiera lo que conteste esa comisión ya se verá

ya le digo desde ahora lo que va a contestar por varias cuestiones una

vista la postura mantenida por el gobierno por la consejera ya le digo lo que va a decir y segundo

la actuación del señor arruebarrena cuándo se ha producido antes de ser

qué va a pasar no se le exige ninguna responsabilidad ya se lo digo yo desde ahora ya se lo digo yo desde ahora y sin ejercer de pitonisa que esa va a ser la respuesta pero como le digo

y no nos tienen que dar explicaciones a nosotros en su caso se lo tendrán que dar a los ciudadanos y señor zorrilla qué mal estilo qué mal ha demostrado usted hoy aquí por varias cuestiones primera

pero no cambiarla en función de lo que diga la persona que interviene eso ya es de mal estilo porque yo en ningún momento he hablado de responsabilidades penales en ningún momento

si hay un proceso penal yo he dicho que al margen de esas responsabilidades yo pido su cese por las responsabilidades en su mala gestión económica que están probadas que las pérdidas económicas están ahí

supongo que a partir de ahora en ninguna institución en ninguna

porque todas las conclusiones son sesgadas políticas y que por lo tanto

que a partir de ahora en aquellas instituciones en las que ustedes están en la oposición no van a impulsar ni van a apoyar ni una comisión de investigación y tercer mal estilo ustedes no son caballito blanco

a nosotros esa idea y a todos los ciudadanos vascos ni son caballito blanco en la corrupción ni son caballito blanco en la buena gestión yo podría hacer aquí un ejercicio porque ustedes también tienen cargos

pero no lo voy a hacer no lo voy a hacer y ustedes quieren vendernos como un mantra verdad que es que el pnv gestiona fabulosamente pues oiga no

y las pérdidas económicas están ahí y yo también he leído las conclusiones y he escuchado a funcionarios que han formado parte

los he escuchado no hablo de oídas me he reunido con ellos y me he leído las conclusiones sesgadas porque son de una comisión de investigación sesgadas pero me las he leído y está claro que ha habido

y esas irregularidades y esa pérdida económica más allá de la aplicación del código ético no es aval ni un buen elemento en el currículum para ser director de una entidad pública y por eso es por lo que pedimos el cese del señor arruebarrena

ni persiguiendo a nadie pero desde luego yo tengo

toda la legitimidad para no tapar las irregularidades y para denunciarlas toda la legitimidad la misma que usted la misma y desde luego

es que la mala utilización de los fondos públicos ha sido notoria los viajes están registrados la publicación en la revista del proyecto ganador un año antes está ahí léase la revista

dos fotocopias y eso es así y todo eso todo eso independientemente de que luego después tengas otro tipo de responsabilidades todo eso le hace no ser merecedor y a la señora consejera yo voy a utilizar una

que es por mostrarles consideración hacia la actividad de control de los grupos parlamentarios y para derivar sus palabras hacia otros aspectos que nada tenían que ver con lo solicitado en los grupos parlamentarios esto es de su iniciativa

nosotros la dimisión no porque para eso hay distintas escalas pero la reprobación sí por lo tanto
mantenemos totalmente las peticiones que van en nuestra enmienda de transacción nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea pastor jauna zurea da hitza

ha hecho el discurso que no correspondía al momento político que estamos viviendo y persiste usted en el error

y parte de un apriorismo que no es cierto nosotros no hemos establecido ningún juicio penal ni fiscal ni de ninguna clase porque

hemos hablado de la propia responsabilidad que tienen ustedes como sostén de este gobierno y el propio gobierno para elevar el listón

que se supone que es lo que pretendía la aprobación del código ético y de conducta y seguimos sin entender por qué no se ha hecho hasta ahora

contra el partido socialista pero si son serios y coherentes reconocerán que desde el minuto uno

nosotros hemos venido diciendo exactamente lo mismo queremos que el gobierno se aplique su código de conducta y en aplicación del mismo determine las acciones a seguir y si lo hubieran hecho probablemente meses antes ese tema solucionado porque el pnv lo que ha hecho es negarse hasta este momento aún mal que a usted le pese hemos conseguido que acepten que eso es lo que había que hacer desde un primer momento ya que sé que ustedes tenían otras expectativas qué quiere que le diga yo no tengo que justificarme ante usted si hago un acuerdo político o no lo hago verdad ni ante la señora llanos tampoco como ella ha reconocido

este tránsito perfectamente orgulloso y una cosa le quiero decir al señor igor lópez de munain

porque usted viene aquí de fariseo y de hipócrita o quiere que le recuerde que ustedes desde el primer momento

o quiere que le recuerde la actitud vergonzante que mantienen con la señora iturbe directora de etb pasteleando con estos señores por detrás o quiere que le recuerde como intentaron

que ellos no querían que se celebrase y eso lo han hecho con su concurso con sus pactos con sus acuerdos por detrás no venga usted por favor

señor pastor yo no creo que me haya equivocado en el discurso

desde que este tema se planteo en esta cámara y sabemos diferenciar claramente las responsabilidades políticas de las penales y usted debiera saber que es así

pues bueno simplemente puntualizarle varias cosas ya lo he dicho ahora que sí

en distintos casos y a mí personalmente me ha tocado también vivir esa experiencia en persona en persona de esa campaña de acoso y derribo y por eso lo conozco muy bien una puntualización también quisiéramos hacer a upyd

que la mesa de la comisión ha cercenado el derecho a que compareciesen unas personas creo que se equivocan la mesa tomó una decisión pero la comisión

acordó por mayoría el que no compareciesen no fue la mesa respecto al partido popular decía la señora llanos que ha sido malo bueno eso es subjetivo yo no voy a entrar en valorar su estilo

nosotros sí porque de las responsabilidades penales deviene en las políticas

y vuelvo a decir que entendemos que el partido popular

está mejor callado respeto a la comisión de investigación que

no va a poder instar a la creación de ninguna comisión de investigación por supuesto que sí pero comisión de investigación con unas mínimas garantías procesales unas mínimas garantías procedimentales y bueno no sé si seremos caballito blanco caballito gris pero lo que está claro es que el partido popular en esta materia es caballito negro respecto

está haciendo meritos para superar al señor maneiro en apelativo que le dedico

se quieren ustedes convertir en los administradores de la justicia universal volviendo como decíamos antes a un sistema inquisitivo de hecho en la comisión dijeron

lo cual es bastante peligroso ustedes hablan

injustas ustedes en este caso ni sentencias ni sentencias se olvidan también deliberadamente de la presunción de inocencia y luego la reclaman en otros temas a diferencia de ustedes nosotros la defendemos la presunción de inocencia para todas las personas no solo de las que les interesan a algunos aquí están juzgando

estar imputada repito habla alegremente de casos de corrupción ya no dice supuestos casos usted se lanza a la ventura de casos de corrupción política

a la corrupción política que es muy grave y como por supuesto hemos dicho hay que combatir y convertir

o moral y de esa creo que ustedes tienen una mochila histórica de la cual les va a ser muy difícil desprenderse no nos pueden hablar ustedes de respeto y ética

conceptos totalmente subjetivos que cada uno los fija donde cree que tienen que estar en función de su educación y valores y creo que ustedes no nos pueden dar a nosotros ninguna lección de respeto

hay dos cosas que no engañan a una sociedad democrática como son las resoluciones judiciales aunque no las podamos compartir y la palabra de la ciudadanía a través de los distintos procesos electorales

y han valorado positivamente la gestión honesta y eficaz del partido nacionalista vasco al frente de las instituciones vascas y en especial basta que se ha mencionado también el ayuntamiento de leioa donde el partido nacionalista vasco

electorales a pesar de sus malas artes y de su juego sucio y por contra han castigado

en este sentido le diré que mientras el partido nacionalista vasco ha mantenido sus nueve concejales los tres partidos bildu y pp han perdido un concejal perdiendo bildu un veinte por ciento de sus votos el psoe más de un veintidós por ciento y el pp más de un treinta y cinco

y que cambien de estrategia esa estrategia la ciudadanía valora el trabajo en positivo y no la confrontación y las malas artes besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

para usted no querer dar lecciones o para acusarnos al resto de ser la inquisición usted nos ha dado lecciones de moral

y de aquello que se le da muy bien al pnv que es creerse el campeón en todo los resultados

hayan cometido corrupción la han cometido la han cometido y es cierto y se puede probar y es demostrable la primera la primera y es un monumento que tenemos que ver todos los que pasamos por el centro de gasteiz es su propia sede que está dentro del caso de miguel

ustedes no pueden negar su propia corrupción ni tan siquiera con los datos electorales ustedes que al resto nos exigen

extra que como buenos gestores ustedes ya lo tienen cubierto porque se supone que eso es lo que son buenos gestores eso es lo que se supone que avala la ciudadanía de ustedes lo que pasa es que día tras día semana tras semana

se está ocupando nos estamos ocupando de que la realidad

y de que todo aquello que ustedes han vendido durante décadas se les esté cayendo y se les está cayendo porque es evidente que el caso hiriko caso epsilon

karrantzako minda caso pinosolo y muchos otros son lo que ustedes

en la comunidad autónoma del país vasco clientelismos y amiguismos y eso es lo que ustedes han favorecido y eso es lo que favorecen sus

aquellas personas que están bajo sospecha de actuaciones irregulares ejerciendo sus cargos de responsabilidad política con lo cual lecciones e inquisiciones usted no puede salir aquí como torquemada a recordarnos absolutamente nada primero mire a su casa

se nos ha dicho también yo creo señor pastor usted me sobrevalora en esos pactos

yo la verdad yo le juro y le prometo que no he estado en ninguno

se lo prometo que haya habido algunos que incluso hayan podido ser un error o que a mí me puedan parecer un error

pero el problema aquí es otro el problema es que aquí cuando jugamos a grande que es donde se ganan las partidas de mus el partido socialista de euskadi se cae mantienen lo que hablan de su discurso desde el minuto uno hasta el minuto noventa el problema es que en el minuto noventa pitan penalti y ustedes lo tiran fuera porque le da miedo a perder ese partido y a ganárselo al partido nacionalista vasco por qué esa es la pregunta que deberían responder qué hay detrás de eso

su voto hoy qué van a conseguir ustedes el sábado con ello consiguen algo modificando su votación de hoy retirando la reprobación de la consejera eso es lo que la ciudadanía quiere saber a cambio de qué han retirado su propuesta y es que sinceramente a chanchulleros

trapicheros yo creo que el partido socialista de euskadi

al resto no sé pero a este grupo le da mil vueltas y así lo han demostrado durante décadas

dutela el decreto ciento siete barra dos mil doce de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos producido entre los años mil novecientos sesenta y mil novecientos setenta y ocho en el contexto de la violencia de motivación política

marcaba como objetivo reconocer la injusticia del sufrimiento de aquellas víctimas así como acabar con el olvido institucional en que estas han permanecido para lo cual aboca paliar este sufrimiento a través de las medidas de reparación que contempla

la injusticia acabar con el olvido paliar este sufrimiento debemos decir que nada de esto se puede verificar a día de hoy tal y como ayer pudimos observar en la emotiva comparecencia de algunas de estas víctimas en la comisión de derechos humanos todavía se ven obligadas a reivindicar todavía se ven forzadas a luchar por el reconocimiento de sus derechos todavía tienen que movilizarse participar en todo tipo de reuniones en comparecencias para no quedar postergadas de la verdad de la memoria todavía ven que sus derechos están a expensas de decisiones de la justicia de recursos del gobierno de madrid de requisitos que siempre siempre dificultan su reconocimiento obstáculos dificultades requisitos que les generan una

victimización viendo como se cierran una puerta tras otra incluso algunos de ellos han tenido que acudir

en búsqueda de justicia una justicia que todavía aquí

ayer en la comparecencia se les trasladó este reconocimiento de palabra por parte de todos los grupos parlamentarios que allí estábamos representados

no es suyo de hecho esa es la tarea que tenemos pendiente aitortza eta erreparazio hori gauzatzeko bidea asmatu

gracias presidenta los socialistas tenemos un compromiso formalizado en esta cámara no vamos a promover debates

en relación a la memoria de lo que ha pasado en este país y sí vamos a colaborar en asentar las bases de la convivencia futura por eso nuestras únicas iniciativas en esta materia han sido para hacer realidad el memorial de víctimas del terrorismo ya se está trabajando en él y la ley de instituto a la memoria que en breve va a dar sus primero pasos

para avanzar sobre los pilares ya construidos en la pasada legislatura y en cuanto constatamos riesgos de retroceso optamos por esperar a que los rezagados

hemos evitamos al máximo la confrontación en este ámbito porque estamos convencido de que revolver todos los días lo que nos separa

y tampoco ayuda a las personas que esperan de nosotros un avance en la memoria en la justicia y en la reparación no estoy muy seguro de que eso haya sido el espíritu de la iniciativa que nos traído hoy bildu

y pidiendo lo ya anunciado que el gobierno vasco presente un proyecto de ley a las víctimas de otras violencias y yo quiero reiterar la posición de mi partido

las otras víctimas no incluidas en la ley de víctimas del terrorismo y que se ha constatado fehacientemente que lo son tienen que tener el reconocimiento y la reparación que merece ese fue el criterio y el camino que en el dos mil doce tomó el gobierno socialista de patxi lópez con el máximo consenso en euskadi y buscando

buscando también el consenso con el gobierno central elaboró el decreto que reconocía a las víctimas de abusos policiales entre mil novecientos sesenta y mil novecientos setenta y ocho

de esta cuestión y probablemente sea porque el actual gobierno no actuó con la misma disposición al diálogo al intentar ampliar sus contenidos y se encontró con un recurso del gobierno central seguido más recientemente de una sentencia adversa del tribunal superior de justicia del país vasco por eso lo que se puede decir

es lo que ya decíamos y hacíamos en junio de dos mil doce que si existe una reparación

a las víctimas de abusos policiales es porque la hizo posible el anterior gobierno y que si ese avance fue posible es porque se realizó con convicción

con discreción y con búsqueda de acuerdos quedaba más trabajo por hacer es evidente pero se cambió el método de la misma forma que se han movido los principios

la búsqueda de consenso la discreción y el rigor jurídico han sido sustituidas por fotos golpes de efecto

sin suficiente cobertura o competencia legal para hacerla

cuando llegó el correctivo judicial y el desencanto consiguiente de una parte de estas víctimas algo que debiéramos evitar porque provoca una frustración

el secretario de paz y convivencia se sacó de la chistera la elaboración de una ley específica para salir al paso ante la opinión pública y utilizó esta expresión porque apenas dos meses antes utilizó esta expresión por algo concreto dos meses antes de anunciar

no se citaba ninguna iniciativa de este tipo y también nos preocupa porque si no se cambia de método

el gobierno puede obtener el mismo resultado que ha tenido con su decreto modificado una ley efectivamente no podrá ser recurrida ante el tribunal superior de justicia por la vía contencioso administrativa ese fue el argumento empleado por el señor fernández

suspendiendo además inmediatamente su aplicación esta es la seguridad jurídica que se ofrece a las personas afectadas con el cambio

la única proviene del acuerdo del consenso del trabajo serio con los agentes políticos y también con el gobierno de españa los socialistas no nos oponemos a una ley

los vacios en materia de memoria reparación y justicia porque lo esencial no es el instrumento sino el método y el espíritu con el que se elabora la norma sea decreto

deberá seguir el mismo camino que ha permitido avanzar hasta ahora con éxito en este campo dos ejemplos la ley de reconocimiento de víctimas del terrorismo del dos mil ocho

en aprobarse en el parlamento vasco desde que la envió el gobierno y eso fue posible porque se había trabajado previamente con intensidad discreción y voluntad de consenso fue esa labor callada de urdir acuerdos la que permitió

en el momento de mayor tensión política de euskadi y eso pasó también con el acuerdo del dos mil doce

cuántas broncas previas cuántos debates parlamentarios sin llegar a un punto común hasta que se encauzó en una ponencia y se buscó con ahínco

eso es lo que defendíamos en nuestra enmienda original y lo que recoge también la que hemos transado con el partido nacionalista vasco una ratificación de los compromisos adquiridos una apelación a la responsabilidad de los gobierno vasco y español y una invitación expresa

de memoria porque si se hace así el acuerdo será mucho más fácil en esta materia es verdad también que el gobierno de rajoy no ha sido precisamente atento con la demanda de reparación de las víctimas de abusos policiales y como ya he dicho los socialistas conseguimos en dos mil doce

no tuviera problemas de recorrido legal no nos gustaría que una ley de reconocimiento a las víctimas de abusos policiales fuera a chocar con la misma piedra

por no haber hecho previamente el trabajo de consenso y concertación política dentro y fuera de euskadi de ahí que en nuestra enmienda transada con el pnv se inste al gobierno a que el proyecto de ley que ha anunciado para sustituir al decreto busque desde el inicio el máximo consenso político social y desde luego institucional

del irreparable daño causado por la violencia y el terrorismo en cada uno tenemos nuestros aciertos y nuestros déficits los socialistas tenemos una historia de participación activa en todas las iniciativas que tienden a garantizar la justicia de quienes han visto vulnerado sus derechos participamos desde el consenso en la ley de reconocimiento de las víctimas del terrorismo la de todas la de todas las bandas terroristas también el gal también el batallón vasco español una ley de la que desgraciadamente dimitió la izquierda abertzale presente en el parlamento vasco pero ausente

el decreto que reconoce a las víctimas de abusos policiales por primera vez en décadas de gobierno el primero que se había hecho nunca y que todavía queda que completar de la misma forma que también desde el gobierno

los últimos fusilados por el franquismo y acudimos al reconocimiento familiar que se les hace cada año

y convivencia se han dado porque asumimos con convicción que nadie debió matar secuestrar torturar

en nombre de ninguna causa que no se debió matar por la misma razón ni a un terrorista ni a un torturador que consideramos vomitiva cualquier justificación

que nadie que murió o resultó herido por excesos policiales puede quedar desamparado por falta de justicia de reconocimiento

queremos que se recupere la senda del entendimiento del consenso de la discreción para que esta legislatura no sea baldía en materia de memoria y convivencia porque justo cuando menos presión ha tenido el gobierno en esta materia es cuando menos

creemos en todo caso que es posible corregir ese camino y está en la mano del gobierno encauzarlo el pasado viernes

hizo algo que le estaban demandando las víctimas del terrorismo y lo hizo bien ahora debe refrendar aquellas palabras con hechos y lo mismo de la tarea de atender con realismo las demandas pendientes de las víctimas de abusos policiales con trabajo con mucho trabajo discreto y sobre todo
con espíritu de consenso eskerrik asko pastor jauna

konpromiso hura berresten dugu verdad justicia y reparación e igualdad de trato a todas las víctimas son principios y derechos universales

y ese ha sido y es hoy también el compromiso del partido nacionalista vasco

mas allá de las dificultades que este proceso de reconocimiento y reparación presenta nuestra voluntad es firme y nuestro compromiso también desde el inicio advertimos esas dificultades los múltiples condicionantes que rodean a esta negra historia

aceptamos entonces en nombre del consenso que el proceso caminase más lento de lo necesario con más cautelas de las que la gravedad de los hechos requería

la parcelación de las víctimas en diferentes etapas en el tiempo de si los abusos se cometían dentro o fuera de un centro de detención acordamos en nombre del consenso la composición y la forma de funcionamiento

tanto en la anterior legislatura como en esta con absoluto rigor y la máxima prudencia así y todo pareciera que el camino se cierra una y otra vez pues bien no vamos a cejar en el empeño no vamos a parar de explorar todas las vías necesarias para reparar en la medida de lo posible una injusticia histórica y una deuda pendiente con todas esas víctimas en el año dos mil quince continúan esperando y no vamos a entrar al trapo del rifi rafe chusco de quién lo ha hecho mejor de quién se ha esforzado más

en la que reiteramos el principio de que no existe causa política ni razón de estado que pueda situarse por encima de los derechos humanos y que todas las víctimas son merecedoras de los mismos derechos

invitamos así mismo al gobierno español a sumarse a las políticas de reparación de estas víctimas desde en consenso en favor del reconocimiento a todas ellas y por último

de presentar un proyecto de ley de reconocimiento y reparación que inspirado en todos los principios que he señalado a lo largo de mi intervención venga a aportar la máxima seguridad jurídica a un proceso que lleva demasiado tiempo retrasándose y que lo haga desde la búsqueda del más amplio consenso social

el mismo esfuerzo de consenso que ha mantenido el pnv

la realización del informe de víctimas de violaciones de derechos humanos en un contexto de motivación política y el decreto derivado del mismo el mismo esfuerzo de consenso

y el resto de grupos que bien van a votar a favor o que espero

a la misma espero que todo esto sea la señal de un nuevo tiempo en el que aparcando las diferencias partidarias seamos capaces de dar respuesta definitiva

gracias presidenta en junio de dos mil doce

de las víctimas de la vulneración de derechos humanos producida entre los años mil novecientos sesenta y mil novecientos setenta y ocho en el contexto de la violencia de motivación política

no fue denunciado por ningún gobierno en octubre de dos mil trece el gobierno vasco ya del partido nacionalista vasco reformuló dicho decreto

esa reforma la abogacía del estado interpone un recurso contra la reforma del decreto el tribunal superior de justicia del país vasco ha tomado en consideración el recurso por lo que sabemos la lehendakaritza recurrirá

el gobierno vasco asegura que el trece de mayo interpuso recurso de casación contra la sentencia del tribunal superior de justicia del país vasco como paso previo al supremo

del recurso planteado por la abogacía del estado contra la reforma del decreto la abogacía del estado recurrió esa reforma asegurando que permitía reconocer a víctimas sin las pruebas necesarias

del gobierno vasco el tribunal superior de justicia del país vasco le ha dado en parte la razón anulando las novedades introducidas por el secretario de paz y convivencia

por no exigir pruebas fehacientes es decir informes médicos oficiales el tribunal superior de justicia del país vasco aprecia que no se garantiza la valoración objetiva y fehaciente de las lesiones de los potenciales beneficiarios y su origen

al admitir cualquier clase de informe médico el gobierno vasco alegaba que una comisión de valoración analizaría todas las solicitudes

ha desestimado por estimar que la comisión carece de los conocimientos médicos adecuados puesto que no se trata de un tribunal médico ni está compuesto por médicos luego

que se alegan el fallo determina además que el baremo que plantea la reforma para reconocer a una persona como víctima y proponer una compensación económica genérico y carece de la definición necesaria para ser considerado realmente un baremo con lo cual vulnera el principio constitucional de seguridad jurídica todo esto

hizo mal las cosas que elaboró una chapuza de decreto y que se equivocó gravemente demuestra creo además que lo que

tratar de atender a unas determinadas víctimas sino directamente la confrontación con el gobierno de españa y creo que puede también

el gobierno vasco pretendía era en fin sacar adelante

un acto propagandístico lo cierto es que rápidamente ha intercedido

como siempre lo hace cada vez que se tratan estas cuestiones para contaminar la iniciativa y ensuciarla con su letra y con su firma

digo esto y creo que el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

claramente deberían recordar quiénes son y qué representan quienes han firmado esta iniciativa y deberían ser exigentes en relación a eh bildu creo que sería interesante que ustedes recordaran nuevamente

o lo dijeran que eh bildu no está legitimada para hablar de derechos humanos es decir que ustedes marcaran una línea roja para diferenciarse

de quienes no lo son dicho esto también quiero comentar alguna cosa en relación a la enmienda inicial del partido nacionalista vasco en esa enmienda es curioso el grupo nacionalistas vascos llama al gobierno de españa a no judicializar y obstaculizar la política de reparación a las víctimas

ya pero si los decretos del gobierno vasco son manifiestamente legales

el tema es su obligación y de hecho el tribunal superior de justicia del país vasco le ha dado la razón al menos en algunas cuestiones que son muy importantes por lo tanto en fin creo que es evidente que el gobierno de españa tiene que estar atento a cualquier a que vigile cualquier tipo de decreto que este gobierno o cualquier otro pudiera

en fin el propio gobierno vasco también lleva permanentemente determinados asuntos al tribunal constitucional por conflictos competenciales cuando considera que

jurídico en fin el gobierno vasco ha anunciado que pretende convertir este decreto en ley

al parecer seguramente en otoño yo en relación a esto quiero decirles algunas cosas y yo les digo que el calendario legislativo lleva un retraso

antes que la elaboración de esta ley y por lo tanto sería interesante que el gobierno vasco atendiera a cuales son los problemas reales de la ciudadanía y a cada problema especifico le confiera la importancia que merece

al grupo nacionalistas vascos y al gobierno vasco que no repitan torpezas como esta que no repitan la torpeza del decreto que ustedes han elaborado que no repitan la chapuza de este decreto estamos hablando

dictadura unos años de la dictadura y estamos hablando de víctimas de excesos policiales que merecen nuestra atención por lo tanto yo les pido

los miembros del gobierno al gobierno vasco al lehendakari a los grupos políticos democráticos que no olviden que estamos hablando de un asunto muy serio

con el máximo consenso posible yo les pido que sean serios y rigurosos

defiendan la teoría del conflicto político que no humillen a las víctimas del terrorismo que busquen el consenso con los partidos políticos democráticos

que decidan impulsar que respeten el ordenamiento jurídico y que respeten las decisiones judiciales a día de hoy por lo tanto y en relación a esta cuestión

gracias señora presidenta buenas tardes ya a todos

tergiversaciones falsedades interesadas suelen ser las señas de identidad de las iniciativas

parte usted en la iniciativa del decreto de reconocimiento y reparación de las victimas de vulneración de derechos humanos producidas entre

para inmediatamente en la propia iniciativa y hoy aquí también hablar de violencia policial en lo que pudiera entenderse

violación sistemática y continuada de los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales

que la policía ejerce reiterada y continuamente la violencia es cierto y lo quiero dejar desde el principio de manifiesto que igual que en otras partes de españa en euskadi no ha sido ajena a actos

pues no se sí es el más correcto pero en cualquier caso han sido actos de violencia hechos violentos que producen violaciones de los derechos de las persona y tras cada vulneración se encuentra una persona una vida que en función de su intensidad provoca mayor o menor dolor y sufrimiento pero que en cualquier caso provoca un daño no solo yo hoy aquí nuestro grupo y yo en otras cámaras hemos reconocido y hemos apostado porque se reconozca

con esas personas aunque es verdad que no sea siempre fácil porque la prueba de las mismas no siempre es fácil pero también quiero distinguir perfectamente

antes de la instauración del estado democrático y después porque en democracia en el estado de derecho consagrado por nuestra constitución cualquier abuso

está perseguida y penada y hay condenas de los tribunales por ello y desde aquí quiero dejar bien claro una cuestión para que ustedes

desde este grupo desde el grupo popular condenamos cualquier abuso que por parte de un funcionario público se haya podido cometer que sea perseguido

que caiga todo el pesode la ley y como he dicho ha habido sentencias de los tribunales al respecto luego el estado de derecho debe funcionar y funciona ante estas vulneraciones absolutamente inadmisibles y nosotros nos congratulamos de que el estado derecho funcione pero es verdad

muchos de ellos con resultados muy trágicos se cometieron

absolutamente inadmisibles que deben de ser reconocidos institucionalmente y resarcidos pero desde luego hay que hacerlos desde la verdad y el rigor como se decía aquí pero también desde la seguridad jurídica es cierto

se interpuso un recurso que por cierto se dijo que era para entorpecer pero que dicho recurso tenía base

pero es que en el año anterior en el año dos mil doce se había publicado un primer decreto un primer decreto que no se impugnó luego si la motivación para la impugnación del decreto fuera políticas se hubiera impugnado también el del dos mil doce y no se hizo

el decreto cuatrocientos veintiséis barra dos mil trece y como digo el tribunal ha venido a dar la razón en varias de las cuestiones que motivaban la interposición del recurso que no era otra que la falta de seguridad jurídica que había tras el nuevo decreto reconocía como ha dicho aquí el señor maneiro que primero

se exige una prueba fehaciente de las lesiones es decir informes o certificados médicos

era contrario a la seguridad jurídica y no tenía las garantías precisas ni el carácter objetivo necesario también

la comisión que ha actuado de forma correcta y su trabajo

tiene que ser sujeto de valorarse positivamente pero sin embargo no es una comisión médica no está formado por médicos

al no ser un tribunal médico ni compuesto por médicos las valoraciones debían de haber sido realizadas si no se quería

desde luego por un médico independiente y con relación a los baremos lo mismo el decreto señalaba

que se considerasen oportunos sin embargo la sala estima que carecen de definición suficiente estos conceptos y que por lo tanto se vulnera el principio de seguridad jurídica

que el decreto era bueno pero no suficiente para garantizar la seguridad jurídica y anunció como se ha dicho aquí que iba a traer una ley una ley que nosotros cuando se traiga

con el máximo consenso posible y fundamentado en conceptos de verdad

reparación y de seguridad jurídica por lo tanto señores de bildu si una de las cosas que ustedes pretendían era que se trajese una ley deberían de haber retirado la iniciativa porque ya se ha anunciado que esa ley se va a traer pero no la han retirado vamos no teníamos ninguna duda de que no la iban a retirar porque ustedes esta iniciativa y ese decreto lo utilizan como un instrumento más en su estrategia

yo hablaba de la verdad y el rigor pero la verdad y el rigor es algo que ustedes no acaban de conocer porque siguen en la misma

incluso utilizar e instrumentalizar a estas víctimas

para abonar la teoría del conflicto pero es que es más usted lo ha dicho aquí las víctimas del conflicto vasco y eso es lo que ustedes persiguen esa teoría del conflicto hacer ver que aquí ha habido dos bandos por una parte eta y por otra parte el estado eso es lo que ustedes pretenden totalmente con todas

decir que había dos bandos y que los dos bandos infringían sufrimiento

no íbamos a votar su iniciativa inicialmente fundamentalmente lo que le digo

nosotros lo hemos dicho y lo quiero volver a reiterar ha habido una serie de violaciones de derechos que deben de ser reparadas que deben de ser reconocidas

con seguridad desde la verdad y desde el rigor pero desde esa misma verdad reconozcan ustedes que no había ningún conflicto vasco que aquí lo que había era una banda terrorista que mataba reconozcan eso tenga la valentía de reconocer eso y de que eta nunca debió existir que no

cuando hagan eso tendrán legitimidad para hablar de determinadas cuestiones mientras tanto

ninguna legitimidad señor arzuaga no les vamos a permitir mientras tanto

y no vamos a aceptar lecciones de ética en materia de derechos humanos por parte de nadie y desde luego muchísimo menos de ustedes que a día de hoy

sola de las vulneraciones de los derechos humanos cometidos por la banda terrorista eta

ordenean señor pastor hay reparación a las víctimas de eta sí las hay a esas que usted denomina otras víctimas no una constatación lo pudimos ver ayer claramente en la comisión de derechos humanos esas otras víctimas con ese mensaje con ese contexto discriminatorio que usted utiliza

utilizó con ellas desde luego no es el que hoy usted nos trae

las víctimas que ayer comparecían dijeron que se habían ilusionado con el decreto que ustedes habían puesto en marcha

han constatado que no les da esa reparación y lo han constatado además porque tiene expectativas realmente realistas razonables y sin ningún tipo de maximalismo parece cierto que usted daban un paso como lo dieron con ese decreto pero ahí acaba todo ahí es donde se quedan

no damos más y eso también nos lo han hecho ver en otros ámbitos y otros lugares de discusión cuando ven que

riesgo la síntesis a la que se puede llegar por la intervención de otras

se quedan ustedes fuera un mal concepto de progreso

nos está costando constatar torturas en el franquismo cuando más o menos todos y todas

no hemos reconocido torturas en el año mil novecientos sesenta cincuenta y cinco años más tarde cuándo vamos a reconocer torturas

del año dos mil cinco en el dos mil sesenta lo tendrán que hacer entonces paco etxeberria está realizando un informe que dice constatar cuatro mil casos en un abanico temporal que llega hasta ayer mismo

entiendo que son términos que son números que son datos que puedan apabullar que puedan hacer cambiar discursos sobre la violencia que hacen temblar muchos pilares del estado de derecho la responsabilidad policial la responsabilidad ejecutiva sobre las decisiones que se le otorgaron a las policías la no actuación de la justicia etcétera pero esa es precisamente la realidad que tenemos que

podemos mirar hacia otro lado no ayer no lo hicimos no al menos los que estuvimos en esa comparecencia presente pnvri esan behar diot ados nagoela

y pp en la línea upyd dice que es una chapuza vamos a ver si puede corregir porque consideramos que hay elementos con los que se pueden

con la visión de que ninguna víctima tenga la sensación de que se está quedando fuera y de que no va a ser reconocida

verdad y de justicia lo que sucede señor maneiro es que usted

ante el sufrimiento de estas víctimas y además amenaza con nuevos recursos ante el constitucional esa insensibilidad y esa amenaza son los elementos que a usted le retratan en esa línea el pp también habla de manipulaciones falsedad falta de rigor

su compañero barrio les trasladó ayer en la comparecencia a las personas que allí departieron no sé si es lo que

les dirá a quienes están computando a quienes están estudiando a quienes están contabilizando estos hechos como el propio paco etxeberria como el propio instituto de la memoria que se va a tener que dedicar investigar sobre estos hechos pero usted señora llanos distingue una época y otra dice que una era así y que la otra es así usted piensa que eso le vale a una víctima

hay tribunales que han investigado los hechos imputables a eta y hay medidas de reconocimiento y reparación a víctimas de eta yo no veo

una época u otra porque sigo viendo tribunales que no investigan que no investigan al estado que no investigan

de seguridad del estado y a estas víctimas se les niega cualquier tipo de legislación cualquier tipo de cobertura para darles no es esto lo que ayer el señor barrio le trasladó a estas

en una reunión en la cual se comprometieron ante algunas víctimas que podrían estar reconocidas en este decreto a solicitar al gobierno de españa que retirara estos recursos ante el

no tienen palabra esto es realmente lo que es grave bale mesedez isiltasuna

a las víctimas cuando hablaba de aquellas otras víctimas que quedaron fuera de las ley de víctimas del terrorismo

y he hablado después de ellas como víctima de abusos policiales y he dicho reiteradamente que merecen el mismo respeto el mismo derecho a la memoria a la justicia y a la reparación

en que eso hay que hacerlo desde el máximo consenso para que tenga toda la seguridad jurídica necesaria porque lo peor

era despertar expectativas que luego quedan frustradas y no creo que sea justo de que usted nos acuse de que dimos un pasito con el decreto

que por prisas la estropearon y hemos perdido mucho tiempo y no me hable usted de prisas porque en fin

parlamento pero si quiere usted le recuerdo que cuando sortu

y lo hizo muy bien y tuvo una salida potro jerezano y después ha tenido una parada de burro manchego

no pongamos acusaciones en boca de nadie que no corresponden yo en cualquier caso quiero quedarme en este pleno

con que parece que se anima un espíritu de consenso y de acuerdo al menos en los elementos básicos mayor que en otras ocasiones me gustaría

al menos ningún voto en contra de la enmienda que hemos pactado con el partido nacionalista vasco me parece que es una enmienda muy ajustada muy ponderada y que recoge perfectamente lo que puede ser el sentir mayoritario

la sociedad vasca y que todos debiéramos de tener creo que seria

a rebatir algunas de las afirmaciones que se han dicho no voy a relatar los informes la oficina de control económico en relación reparación de estas víctimas que se encontró este gobierno cuando entró ni muchas otras cosas que explicarían

de la sesión de hoy es que se está produciendo o se puede producir un nuevo tiempo como

haciendo votos por un nuevo tiempo en el que aparcando las diferencias y aparcando incluso nuestras propias historias y sinergias

lo que realmente esperan estas víctimas de sus representantes que demos cumplida respuesta a sus derecho de verdad justicia y reparación y creo

a dar un pequeño aunque pequeño importante paso en esta sesión parlamentaria de hoy y quiero aprovechar mi segunda intervención para agradecer el voto de los grupos que

van a apoyar con su voto bien en su totalidad o parcialmente
enmienda de transacción porque creo que es una fotografía de ese nuevo tiempo nada más gracias eskerrik asko iturrate jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

de enervar los ánimos de nadie y sin romper el debate sosegado

me ha acusado de amenazar y de insensibilidad y precisamente que lo diga usted no que diga usted que yo amenazo o que yo soy insensible es ciertamente curioso yo no amenazo yo lo único que he dicho es que efectivamente aquí se ha producido un recurso por parte

no soy yo quien recurre es el gobierno de españa y hay una sentencia del tribunal superior de justicia del país vasco que hay que atender eso es lo único que he dicho yo he recordado qué es lo que ha ocurrido en los últimos meses

de ahora haga bien las cosas esto es lo que yo he dicho yo no he demostrado tampoco ningún tipo de insensibilidad la insensibilidad suele mostrarla usted

en relación a todo lo que tiene que ver el terrorismo de eta y a las víctimas producidas por eta

porque da la sensación y creo que es más que una sensación de que usted trae este tipo de temas en fin para calentar el ambiente y para incordiar y nunca lo hace para tratar de que

trata de adelantarse al gobierno vasco cuando en este caso concreto el gobierno vasco ya había anunciado la presentación de una ley en fin el insensible en este caso es usted por estas dos cosas en relación

a este tipo de asuntos en lugar de buscar el máximo consenso en lugar de esperar qué es lo que hace el gobierno viene aquí se adelanta y trata de utilizar

lo hemos visto todos es decir no ha habido un ánimo constructivo

planteamientos aquí cada uno tenemos puntos de vista distintos cada uno tiene

preferidos algunos damos más importancia a otros pero sí que da la sensación de que usted cuando ha traído este tipo de temas nunca lo ha hecho con ánimo constructivo

meter el ojo a alguien siempre siempre ha sido así pero en fin únicamente para contestarle porque ya digo que tenía intención de intervenir en este segundo turno ya digo yo solamente he dicho que se trata de un asunto sensible que estamos hablando de víctimas

que merecen nuestra atención y que por lo tanto el gobierno vasco tiene que ser serio tiene que ser riguroso tiene que hacer bien las cosas tiene que buscar el máximo consenso preferiblemente evidentemente con los partidos políticos democráticos tiene que buscar el máximo consenso con el gobierno de españa

que exista y pueda producirse la máxima seguridad jurídica tiene que respetar el ordenamiento jurídico todo esto es lo que yo he dicho creo que en definitiva he hecho un discurso en fin

creo demasiado extrañas y dicho esto votaré a favor del punto uno de la iniciativa y no me opondré a ninguno de los otros dos

gracias señora presidenta es verdad que tanto el señor barrio como yo que estuvimos en esa reunión nos comprometimos a hablar con el gobierno de españa y lo hicimos pero es verdad que existen razones de seguridad jurídica y que falta la seguridad jurídica en este decreto lo ha reconocido

disposiciones normativas que son buenas que garantizan derechos a los ciudadanos vascos son recurridas por cuestiones competenciales por cuestiones jurídicas luego a esas personas que se les reconocen esos derechos

por qué se interponen esos recursos y dicho esto

vergüenza no conoce lo que es ese concepto no lo sabe no sabe lo que es la vergüenza y no lo sabe por muchísimos

manipulado bueno pero no nos extraña porque lo hacen siempre ha manipulado total y absolutamente mi intervención

lo he dicho lo mismo que el señor barrio exactamente lo mismo que estas víctimas

reconocido su sufrimiento reconocida la violación de los derechos humanos y resarcida

lo mismo lo mismo lo mismo que el señor barrio claro que tiene que ser reconocido

criterios de seguridad jurídica sin generar falsas expectativas pero reconocido y claro que hay que distinguir claro usted habla de un estado de derecho pero vamos o sea es que ustedes es que para ustedes el estado de derecho

pero normal que sea una filfa teniendo en cuenta que siguen sin condenar a eta en el año dos mil quince pues normal normal en el estado de derecho que tenemos y que está consagrado en nuestra constitución cuando se cometen torturas

a las de eta que en su manual llevaban perfectamente que lo primero que había que hacer era interponer una denuncia por torturas esas son las que no son investigadas esas se persigue y que caiga lo he dicho aquí que caiga todo el peso de la ley

porque si nadie puede cometer una violación de derechos humanos pero quien es un funcionario público menos todavía menos todavía porque tiene que garantizar el cumplimiento de la ley

y dicho esto usted el que no tiene ninguna sensibilidad

es usted que utiliza a estas victimas como le he dicho para minimizar

para minimizar y querer llegar al empate infinito de que todos

por mucho que lo repita una y otra vez aquí no había dos bandos había uno una banda terrorista que mataba extorsionaba secuestraba y que privó de la libertad y la democracia a este país durante muchísimo tiempo y a día de hoy toda esa bancada

en todas y cada una de las ocasiones como le digo sensibilidad

mientras tanto menos lecciones a los demás menos lecciones ustedes menos que nadie porque le repito lo que le dijo el señor barrio estas víctimas tienen que ser reconocidas y reparadas su sufrimiento pero de la misma forma que yo digo claramente eso y todo nuestro grupo diga usted aquí eta nunca debió existir que no lo va a decir porque incluso se va a abstener en el primer punto por qué porque dice

puede ser causante de muerte y de asesinatos por qué porque la de eta sí

ese día nos da lecciones a los demás mientras tanto guárdese sus vergüenzas eskerrik asko llanos andrea